eguerdi on guztioi para ejercitar el derecho de autodeterminación los pueblos del estado debían haberse constituido previamente en territorio autónomo de acuerdo con la constitución

a propuesta de una cuarta parte de sus miembros su aprobación exigía el voto de la mayoría absoluta de estos la aprobación debía someterse a referéndum de la población afectada y la decisión de constituirse en estado independiente requería el voto afirmativo de la mayoría absoluta de cada territorio

enmienda al título octavo de la constitución española como vía de incorporación del derecho de autodeterminación por parte de francisco letamendia ortzi

cuando hace un mes escasamente un mes este parlamento declaraba que ante un nuevo tiempo de convivencia política en euskadi

compartir determinados principios uno el pueblo vasco constituye un sujeto político con derecho y capacidad para decidir sobre su futuro a ser consultado y a que su voluntad democráticamente expresada sea respetada

pero supongo que mantendrá la misma posición pero mayoritariamente

esa existencia de un pueblo con derecho a decidir se puede seguir negando pero existe es que es real aportamos

la negociación en los más amplios acuerdos entre las fuerzas políticas o en su defecto en el respeto a la voluntad mayoritaria libre y democráticamente expresada

y alguien puede decir no no pero dentro de la legalidad pues vayamos a la legalidad y cuando en este país también determinadas informaciones políticas determinadas informaciones políticas un tiempo

cuando hablábamos de los mecanismos que permitan a la ciudadanía vasca a adoptar libre y democráticamente decisiones en torno a su futuro político e institucional

a nadie hoy pero bueno es un texto que en el pasado hemos trabajado y en el que hemos coincidido cuando se dice nos comprometemos a defender que las decisiones

sean respetadas por las instituciones del estado esto es lo que decíamos

y se avanza se avanza se dice dichas decisiones se adoptarán en ausencia de cualquier tipo de violencia y coacción siguiendo las normas y procedimientos legales y respetando los métodos democráticos y los derechos y las libertades de la ciudadanía se establece el procedimiento y se añade voluntad política

se refieren a los vigentes en cada momento pudiendo ser modificados en el futuro para que no sea una limitación a la voluntad popular sino garantía de su ejercicio yo creo que se expresa

si es la voluntad es la legalidad o se actúa en simbiosis entre legitimidad y legalidad

por eso nosotros sentimos que el último debate la apelación al principio democrático que hacíamos en el tercer punto quedara

en un empate inicial y con tres empates consecutivos

con una mayoría significativa de esta cámara porque el partido nacionalista vasco recuerda distintos momentos de lo que han podido ser intentos de modificación de la constitución española realmente la iniciativa institucional de este parlamento

aprobado el treinta de diciembre del dos mil cuatro y defendido en el parlamento

el suyo no llevaba directamente una modificación constitucional se entendía que existían y existen perchas perchas jurídicas sobre las que colgar

interpretación teniendo en cuenta las adicionales derogatorias etcétera etcétera apelación a los derechos históricos se entendía que existía esa percha

hacia un acuerdo de convivencia política el dos mil once en agosto

el partido popular y el partido socialista el partido nacionalista vasco

presenta una iniciativa de modificación del texto constitucional incorporando proponiendo que se incorpore como modifica la constitución española incorporando el derecho de autodeterminación en base a la declaración aprobada el quince de febrero de mil novecientos noventa en esta cámara yo creo que

upyd quiere acotar el territorio del debate diciendo

y los derechos de los vascos estarán sujetos a ese principio de igualdad que nos iguala a todos como españoles

de este pueblo porque está subsumido en otro sujeto político que es superior y que no admite que no admite nuevos sujetos políticos

en la ponencia de autogobierno hemos escuchado muchas cosas

algunas compatibles que pueden permitir un desarrollo un recorrido el partido nacionalista vasco piensa que

mas la apelación a cómo se deben tramitar las posibles reformas en esa apelación a la legalidad que estos son

que no he inventado yo ninguno no he escrito yo ninguno

en las conversaciones no ha escuchado la primera parte de mi intervención señor ares sí y papeles y creo que dan pistas arrojan pistas para que también desde esa ponencia de autogobierno o si en su caso alguien o

un procedimiento de modificación de la constitución española para que de forma mayoritaria también este parlamento en nombre del pueblo a quien representa también su propuesta de modificación yo creo que pronunciamientos existen no son vinculantes

ninguna doctrina ni pronunciamiento que vincule porque estamos hablando de proposiciones no de ley

pero sí tuvimos un proyecto de ley de ley aprobado por esta cámara en diciembre de dos mil cuatro que fue

y ni siquiera fue atendido no fue atendido fue rechazado y era una fórmula una expresión

hay tiempo hay tiempo para buscar nuevas formulas pero desde la voluntad mayoritaria

me gusta que los grupos políticos bajen a la tribuna y defiendan sus propuestas me gusta

lo que considere cada cual en función de lo que considere que son propuestas necesarias para la sociedad

o que determinados políticos determinados representantes políticos durante demasiados años hayan estado o incluso hayamos estado

una postura excesivamente proteccionista como con miedo de defender cuales son nuestras propuestas eso no me gusta y creo que hay que romper con eso que baje el señor egibar y nos cuente

de siempre que defienda sus propuestas me parece bien pero yo también quiero hacerlo y no me gusta aquellos representantes políticos que

de esto no debería hablarse no me gusta la pereza

que ya lo explicaré allí no me gusta somos parlamentarios y me parece razonable que aquí cada cual defienda

cuáles son las medidas que en función de cada cual considera que son necesarias poner en marcha me gusta por lo tanto el trabajo parlamentario

igual es un error y no me debería gustar tanto y me debería dedicar a otras cosas pero en fin

y defender lo que creo porque unos y otros o algunos más que otros me han venido a decir que

que no es la forma que no es el modo que es mejor trabajar estos asuntos de forma discreta que no hay consenso suficiente

pues yo creo que son asuntos importantes señor sémper creo que este es un asunto importante cómo no vamos a hablar de la reforma de la constitución española o de la reforma del modelo de estado en este parlamento cuando nos afecta directamente a nosotros cómo no vamos a hablarlo

tantas veces como sea necesario le parece que no es una cuestión importante no le parece un asunto relevante que además nos afecta directamente a los vascos y alguno me reclama humildad humildad toda

nuestras propuestas abiertas lógicamente al resto de partidos políticos muy difíciles de llevar a cabo pero precisamente algunas de estas propuestas ya se están abriendo paso

reforma constitución española ir hacía un estado federal supresión de las diputaciones fusión de municipios igualdad ciudadana igualdad fiscal creo que son ideas que se están abriendo paso y yo quiero insistir en ellas lo otro es inmovilismo lo otro es no hacer nada lo otro es venir al parlamento a pasar el rato el señor sémper por ejemplo me dice es imposible llevar a cabo estas propuestas

sí sí usted ha dicho esto que usted plantea es imposible si consideramos si nosotros consideramos que son medidas necesarias y razonables por qué es imposible que no hay consenso evidentemente no hay consenso el tablero político está roto

pero estas son nuestras propuestas estamos aquí para defenderlas no solamente para criticar lo que plantean los demás y es lo que yo he hecho y he explicado con perfecta nosotros no queremos imponer nada no podríamos imponer nada ninguno podría imponer nada tiene que haber el máximo consenso y pienso que estas son las medidas que habría que poner en marcha cuándo me preguntaba alguno cuanto antes cómo pues con los procedimientos legales establecidos y buscando el máximo consenso

no es partidismo hombre lógicamente yo bajo aquí a defender las ideas de upyd no voy a defender las ideas del partido nacionalista vasco y estas ideas

absolutamente necesarias y que tienen que ser tomadas por el conjunto de los ciudadanos españoles porque el derecho a decidir efectivamente existe y para tomar determinadas medidas como puede ser la reforma de la constitución española lógicamente tiene que llevarse a cabo

en esa decisión hay algunas decisiones que únicamente nos incumben a nosotros y en el ámbito de nuestras competencias las decidiremos nosotros otras no otras tienen que

evidentemente y esta es una de ellas la reforma de la constitución la reforma del modelo de estado pero creemos que estas son las medidas absolutamente indispensables para mejorar la vida de la gente qué a ustedes no les gustan

qué ustedes consideran que no hay que cambiar nada perfectamente respetable qué ustedes consideran que la constitución española es intocable perfectamente respetable incluso es respetable

en todo caso son estas y no es partidismo venir a un parlamento

por lo tanto menos pereza menos inmovilismo menos mirar al pasado

en fin el modelo de las autonomías si hay que reconocer

bien pero estamos en un proceso de cambio hay que mirar hacia el futuro y nosotros pensamos que esto es lo que debería hacerse buscando el máximo consenso lógicamente y en beneficio del conjunto de la ciudadanía no es en beneficio de upyd es en beneficio del conjunto de la ciudadanía ya verán ustedes

antes o después se van poniendo en marcha gracias eskerrik asko maneiro jauna

ni a ningún parlamentario de esta cámara la legitimidad de presentar en este parlamento lo que quiera

ser útiles con las cosas que se discuten en esta cámara y en un tema como se suele decir en el que jugamos con las cosas de comer creo que hay que ser lo suficientemente prudente inteligente y a veces discreto a la hora de abordar estos temas para que puedan llegar a buen puerto

un proyecto político que gustará más o menos a nosotros nos parece que es bueno nos parece que es el mejor de los que hay encima de la mesa pero por supuesto estamos dispuestos a discutirlo es verdad que aquí también como recordaba el señor egibar hace escasamente un mes ustedes presentan ahora ese

proyecto federal simétrico y los señores de bildu pues hablan del derecho a la independencia

en el mismo debate porque aquí tenemos además un problema específico y es que aquí hay determinados señores como el señor arraiz que tiene un sentimiento de pertenencia muy concreto y una identidad muy definida también en el pnv al menos el señor egibar sí presume de que la tiene

yo tengo otro sentimiento de pertenencia distinto que no es excluyente respecto de lo vasco y de lo español el suyo sí y yo respeto el suyo y le pido que usted respete el mío

debemos de intentar conciliar todos los sentimientos de pertenencia que existen en este país que son muy diversos y en su partido también hay diversas identidades en el sentimiento de pertenencia y diversos límites

hacer todo lo posible para forjar un proyecto común con el resto de españa porque pensamos que es más eficaz para los intereses de los ciudadanos vascos yo entiendo que ustedes tengan

pero entiendan también que de alguna forma habrá que conciliar ambas posturas el señor arraiz decía no es que ustedes son inconcretos en su propuesta no si usted espera encontrar en nuestra propuesta el ejercicio del derecho a decidir no lo va a encontrar nunca porque esa no es nuestra propuesta política y no la vamos a defender nunca

derecho de autodeterminación es una reivindicación política muy legítima pero no es ningún derecho ni está reconocido como tal en ninguna constitución del mundo ni en el derecho internacional tampoco

de la eficacia y del interés para el bienestar de los ciudadanos vascos y del resto de los ciudadanos españoles

sin maximalismos y sin ánimo de usar esto como un elemento de agitación política si es que de verdad pensamos todos que hay que tratar de conseguir un marco mejor

para eso hay que encontrar un mínimo común denominador lo más amplio posible

y solo les pido a los demás que tengan al menos el mismo empeño eskerrik asko pastor jauna euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

gracias señora presidenta mire señor maneiro a mí lo que no me gusta es vivir en una noria

siempre permanentemente contra un muro que es lo que a usted parece que le gusta a mí lo que no me gusta son los debates que no conducen absolutamente a nada porque hay demasiados problemas ahí fuera como para que estemos aquí jugando a cositas de políticos

usted sabe perfectamente cuando presenta esta moción cuál es el resultado de la votación porque además usted participa en ponencias parlamentarias donde precisamente estamos hablando de estas cosas con mucha seriedad y con mucho rigor y donde vamos a seguir haciéndolo

la democracia contemporánea porque lo que está haciendo es un juego partidista

porque sabe usted que este debate no nos lleva a ningún sitio a usted y al resto de las formaciones políticas les lleva a mantenerse en sus posiciones

claro que es un debate importante faltaría más tan importante que sorprende mucho que las propuestas de resolución que me he tomado la molestia de leer

donde este debate sí tiene sentido en febrero de este año no se habla ni tan siquiera propone lo que usted está proponiendo aquí no no léase las propuestas de resolución

de upyd ni tan siquiera plantea lo que está planteando aquí y nos viene aquí con la monserga de siempre

que este debate es importante pero si donde los tienen que plantear no lo plantean

a dónde nos quieren llevar para qué estamos en la ponencia de autogobierno

porque hemos oído los mismo argumentos que hemos oído treinta y ocho mil veces en esta cámara y que nos han llevado todos al mismo sitio

abra los ojos quizás el camino no es el correcto el que estamos haciendo

no es el correcto vamos a darnos otra vez contra el mismo muro

eso es el debate edificante pues a mí darme contra un muro a nosotros darnos contra un muro nos produce una pereza infinita

queremos crecer evolucionar que esta sociedad se modernice que nuestras instituciones

se modernicen claro que sí encima en un alarde de ausencia de humildad extrema dice ya verán ustedes ya verán ustedes

claro y otras no y algunas que plantean estos señores también

en sentido positivo quiero decir claro o usted pretende decirnos

lo que ha venido usted a enumerarnos aquí se lo ha inventado usted lo ha incorporado upyd a la política moderna hemos tomado nota todos los demás el partido nacionalista vasco el partido socialista el partido popular recién llegados

esas propuestas o algunas de ellas se incorporaran en una hipotética modificación del estatuto o de la constitución española pero es que hay que aguantarle algunas cosas señor maneiro con mucho respeto pero es que alguna vez

y no es pereza señor maneiro lo que tenemos el resto lo que creo insisto y piense en esta idea que no es muy complicada es que hay que intentar buscar otro camino hay que hacer otro recorrido porque el que hemos utilizado

y claro que hay que retratarse y lo hemos intentado en muchas ocasiones y lo vamos a ver en los próximos meses

señor egibar poco a poco se nos va retratando poco a poco ya empieza a mencionar cada vez más el plan ibarretxe

si el plan ibarretxe al que ha vuelto hacer hoy referencia el señor egibar es el punto de partida del partido nacionalista vasco

así que aprovecho perdone ya que le quite protagonismo y le pregunto

señor egibar y lo hago porque usted lo ha puesto sobre la mesa en su intervención

tengo pocas esperanzas de que vaya a responder pero lo voy a intentar voy a intentarlo el plan ibarretxe

para un debate sobre una hipotética modificación del estatuto de autonomía o incluso posibles reformas constitucionales

en la próxima fase de la ponencia de autogobierno muchas gracias eskerrik asko sémper jauna

es cierto que hay diferentes sentimientos de pertenencia o de identidad nacional en este país pese que a algunos no se nos acepte el nuestro propio y se nos imponga uno ajeno que es la gran diferencia que existe entre usted y yo yo a usted le acepto sus sentimiento de pertenencia y su identidad nacional no tengo ningún problema con que usted sea español

que le corresponden siendo un ciudadano español en euskal herria

sin embargo yo soy vasco solo me siento vasco y no tengo garantizados todos mis derechos en mi propio país esa es la gran diferencia entre usted y yo en este país y en este momento los sentimientos de pertenencia son plurales por supuesto que sí y luego hay proyectos políticos que son distintos el suyo es el de que esta parte de país sea españa me parece legítimo y respetable

es que esto sea un país independiente llamado euskal herrria y también me parece legítimo y respetable pero usted y los suyos

lo respetan porque imposibilitan que se pueda llevar a la práctica

que viene reflejado en su constitución en la constitución española

el papel de garante de la unidad indisoluble de la nación española esa es la gran diferencia

donde usted el otro y el de más allá nos podemos encontrar

perfectamente legítimo y respetable pero donde podamos decidir único límite el único límite tiene que ser la voluntad popular es decir

y que podamos decidir cuál tiene que ser nuestra relación con el estado español

así paso a responder al señor borja sémper que si no me pregunta a mí después le preguntan al lehendakari si andamos

en primer lugar aquí el treinta de diciembre del dos mil cuatro se aprobó una ley

que siguiendo la vía de reforma

en madrid se defendió defendió ibarretxe en nombre de este parlamento y

o desconoce no lo sé qué es lo que dice ese proyecto a tenor de algunas de las manifestaciones que hace porque

cuyo depositario es este parlamento no el pnv ni ibarretxe que ya no está

no vincula a nadie luego en los trabajos de la ponencia cada cual expone y presenta lo que quiera

están los principios no estamos en la articulación de un texto

el partido nacionalista vasco usted no deduce exactamente cuáles son los principios sobre los que pretende que se articule la nueva propuesta si le acabo de leer los dos principios pueblo vasco sujeto político

a que la ciudadanía vasca sea consultada y que lo que libre y democráticamente

principio democrático le voy a decir más

si los partidos del estado español los grandes

bien sea el partido popular partido socialista podemos y otras fuerzas no entran en vías de profundización democrática

en la prohibición o en la amenaza y si a una posible o potencial oferta nuestra de este parlamento que con el mayor de los consensos posibles pero sin derecho a veto por parte de nadie se ultimara

si se desatienden todas esas iniciativas

el treinta de diciembre del dos mil cuatro como una oportunidad perdida fíjese lo que le estoy diciendo el no haber tendido la mano cuando con un proyecto

intentando y con el objetivo de negociar y se pega un portazo es posible que alguno se arrepienta en el tiempo

por qué no atendimos aquella propuesta y esto no me lo estoy inventando porque ya le he escuchado a alguno de su partido y también a alguno del partido socialista en madrid que cuando

conforma un proyecto y no se le atiende se le rechaza

lo mismo y se le rechaza y se le reforma es posible que los escenarios que llegan los sobrevenidos

desde esa seguridad al parecer que tienen los grandes partidos nacionales españoles

para desarrollar sobre esas bases un texto con el máximo consenso y a falta de mayorías o consensos absolutamente unánimes

es que alguien practique el derecho a veto permanentemente eskerrik asko

gracias señora presidenta buenos días a todos

presentamos en esta cámara una interpelación a la consejera de seguridad relativa

porque considerábamos que dada la contestación que este plan y la estructura derivado del mismo había tenido y dado el carácter dinámico del mismo cuando se presentó queríamos conocer si dicho plan iba a sufrir alguna modificación pero la consejera haciendo

consideró que dicho plan era perfecto que la estructura era perfecta que no había traído ninguna disfunción y que por lo tanto no se plantea hacer absolutamente nada y es por ello por lo que hemos presentado esta moción porque como se ha dicho aquí antes después de una interpelación

no presentar una moción cuando se ve que realmente hay una voluntad por parte del gobierno

presentar la moción para que la cámara se pronuncie y porque desde este grupo consideramos que lo que la consejera manifestó en esa interpelación no se corresponde

que la organización derivada del plan es manifiestamente mejorable y que por lo tanto es necesario hacerse este planteamiento en ese pleno se me tildó de representante sindical en esta cámara bien será porque yo escucho a los sindicatos más que la propia consejería porque les tengo

porque precisamente la presentación de la nueva estructura del departamento y del plan horizonte dos mil dieciséis se hizo en primer lugar a la prensa ni tan siquiera los interesados ni tan siquiera en esta cámara no se hizo primero a la prensa el plan giraba en torno a cuatro ejes

prevención activa que luego me referiré a ella mejora continua que claro que es

y compromiso y cohesión interna que creo que con la actuación del departamento cada vez se está consiguiendo menos y se basaba en misión visión y valores valores que debían de ser la cercanía la confianza el compromiso el equipo y la evolución y parecía como que estos valores nunca hubieran existido en la ertzaintza y a nuestro juicio los tiene desde hace mucho tiempo nuestro grupo

estamos totalmente de acuerdo que teniendo como objetivo garantizar la seguridad de la sociedad vasca se quiera mejorar la atención y la seguridad ciudadana la investigación la inteligencia policial la prevención y la protección que es bueno perfeccionar la forma de actuar siempre

porque como dije es bueno que los cambios sean participados y asumidos por quienes los tienen que aplicar en última instancia que son los agentes conseguir

tener en cuenta sus aportaciones de los que están sindicados y de los que no lo están y también contar con las aportaciones de los ciudadanos pero esto no se ha hecho porque ya el plan como dije arrancó mal porque se impuso además se ha considerado que solamente el departamento puede hablar de organización

los propios agentes implicados ni tan siquiera los que lo tienen que aplicar los sindicatos que representan a muchos de esos agentes tiene a los sindicatos

en contra y tendremos ocasión de que expongan precisamente cuáles son sus quejas sindicales en esta cámara pero como le he dicho antes y como he dicho antes aquí como le dije a la consejera en su momento cuando se presento el plan el plan era dinámico

es que cuando algo se ve que tiene disfunciones y que es posible mejorar introducir esas mejoras introducir las correcciones para que

y en esta cámara en esta cámara en comisión hemos escuchado verdaderas enmiendas a la totalidad en el plan y si no llegaban a ese carácter de enmienda a la totalidad desde luego sí que hemos escuchado la necesidad de introducir modificaciones y es lo que proponemos hoy aquí nada más que eso en la moción que hemos

porque las hay y muchas aunque no se quieran reconocer y así como digo como he dicho antes se puso de manifiesto en esta cámara porque el plan tenía mucho y de propaganda se implantó además de forma impuesta precipitada e improvisada y no se ha dotado de los medios suficientes cuando se puso en marcha ni tan siquiera estaba configurada

ni cómo iba a funcionar eso sí se empezaron a quitar y a desaparecer unidades empezó

problemas porque era necesario sobretodo dar la imagen de la presencia en la calle como he dicho no un sindicato no dos todos los sindicatos que comparecieron en esta cámara todos dijeron

que funcionaba antes pusieron de manifiesto que los cambios lo que habían traído es que la acción

de lo que era antes y claro ya no se sostiene eso de que las críticas de los sindicatos era porque había elecciones sindicales porque las elecciones sindicales pasaron y las críticas siguen estando ahí porque la gestión del valioso capital humano que constituyen los agentes de la ertzaintza es pésima tan pésima

que es difícil de conseguir y es esa unanimidad sindical unanimidad en críticas

lo que la consejera denominó racionalizar la gestión en román paladino recorte del servicio porque cuando se trata de otra administración estarían hablando de recortes sin ningún tipo de dudas ahora eso sí cuando se hace por parte del gobierno vasco se tira del manual de las perífrasis verbales y aquí tenemos para llamarlo de distintas formas bien la cercanía de uno de los puntales del plan

que el objetivo era ganar en cercanía pero no es así la gestión compartida no trae mayor cercanía porque en muchos casos ha provocado desatención

una unificación encubierta con un único objetivo un objetivo puramente económico y que lejos de mejorar el servicio prestado de la ciudadanía lo ha empeorado y ha producido un déficit del mismo otro de los puntales prevención como digo otro de los ejes sobre

pero la prevención ha empeorado y ha empeorado porque lo que se ha pretendido no es

porque la prevención se consigue patrullando se consigue patrullando con agentes uniformados y con agentes no uniformados pero qué ha sucedido que priman

y cuál es la razón evidente la de siempre la imagen por qué porque a los que patrullan uniformados se les ve más

pero a veces los no uniformados los askatus son infinitamente más eficaces para la prevención del delito

los uniformados pero claro como digo la imagen impone que se vea

y así se expuso aquí también en comisión que los vehículos tengan que llevar los rotativos siempre encendidos y siempre tengan que avisar en su presencia y que por ejemplo

en qué pabellón están y claro vía ancha para entrar en el resto de los pabellones porque como digo la imagen y la estadística son las principales preocupaciones por eso también por pura estadística se hacen controles sin sentido aquí se quejan de los controles

porque se ha dicho así que a una misma persona que se le controla por la mañana cuando sale de su casa y por la noche cuando llega a su casa es el más controlado de todo euskadi controles de dispositivos de retención infantil es decir para que nos entendamos todos las sillitas de los niños de los coches

una hora muy común en la que todos verdad llevamos a nuestros hijos a pasear

y para ayudar también a la estadística a la hora de registrar los delitos se tiene que registrar de distintas maneras lo que son robos si no son consumados se registran como delitos de daños porque

a la ciudadanía mucha menor preocupación la investigación

y en eso estamos de acuerdo con mayor formación y con mayor dotación de medios personales y materiales creo que en eso todos estamos de acuerdo todos los grupos políticos

pero claro lo que ocurre es que se han invertido las personas de investigación porque la investigación comienza con la denuncia del hecho delictivo y claro en este momento para atender a quien denuncia el hecho delictivo hay un cuarenta por ciento menos de personal de lo que había antes y eso implica que los ciudadanos en muchísimas ocasiones tienen que esperar muchísimo tiempo o tienen porque se les dice que vayan a otra comisaría o que vuelvan al día siguiente y yo lo he dicho en muchas ocasiones no me parece normal que se le diga a un ciudadano

oiga no le puedo atender hoy vuelva usted mañana porque lo que quiere es denunciar cuanto antes y ahora parece que se va a poner un nuevo servicio

la cita previa para denunciar pero claro esto de la cita previa para denunciar no es por la mejora del servicio no esto es

vuelva usted mañana o váyase a otro sitio a denunciar que aquí si no va a tener que estar esperando dos horas y deben ponerse medios también para que

su trabajo y por ejemplo en este momento hay problemas con las inspecciones oculares a quien ha sufrido por ejemplo un delito se le dice no mueva nada de la escena del delito hasta que nosotros vayamos y tiene que tener cerrado un negocio cinco horas porque tardan cinco horas en llegar y por ejemplo otra cosa que funciona mal que se ha dicho que funciona mal es el traslado de los presos antes se hacía desde los tres grupos que estaban en las comisarías donde estaban los centros penitenciarios

que tiene que hacer en ocasiones cuatrocientos kilómetros cuando antes hacía cuarenta es decir diez veces más

que esto ha empeorado el servicio tanto del traslado de presos como del propio

pues creo que no es de recibo queno se reconozca porque claro cuando

el orden público de prevenir incidentes graves de atajar los disturbios cuando los pueda haber en ocasiones se solicita y se mandan

es verdad que a veces ese no envío de la brigada móvil es absolutamente intencionado porque haciéndose eco de lo que

porque solo a veces el hecho de que esté eso ya es prevención del altercado tiene que estar a veces ese no envío o no envío en forma suficiente es absolutamente intencional pero en ocasiones no es intencionado no se manda porque no hay más

se hacía de forma muchísimo más eficaz y toda esta ineficacia se refleja en el número de quejas que ha aumentado

poner una queja no siempre es fácil no es fácil ni para el ciudadano ni es fácil porque muchas veces cuando los agentes le dicen al ciudadano ponga usted una queja luego el propio investigado es el agente que le ha dicho a ese ciudadano ponga usted una

pegas para poner las quejas las quejas han aumentado un treinta y uno por ciento y el mayor porcentaje de aumentos es precisamente

atenderles por ello dado que no vimos ningún viso de que por parte del propio departamento se vayan a reconocer estas disfunciones

era como les gusta a algunos decir también aquí puro postureo porque de dinámico nada inmutable como es inmutable y no negociadora la actitud del departamento con relación a los derechos laborales de los agentes dado que no vimos esa intención por parte del departamento es por lo que hemos presentado la moción una moción

y que si nos creyéramos el carácter dinámico del plan sería perfectamente asumible que es que se analizasen las disfunciones que se tuviesen en cuenta las aportaciones

se modificase el plan y la estructura para que sirviese al fin último que debe de tener para que sirva a ese objetivo de dar seguridad a la ciudadanía

porque si no ya sé lo que va a suceder su trabajo y profesionalidad queremos ponerlo totalmente en valor porque hacen un trabajo impecable a pesar de lo mal dirigidos que están pues bien para que cuenten con una estructura y con unos medios adecuados para poder hacer su trabajo

honekin giza eskubideen errespetuaren marko orokor batekin el plan horizonte dos mil dieciséis propone una idea fuerza

sin embargo no se detiene a explicar por qué se había producido esa lejanía si no era para echar la culpa

una vez acabada la pretendida disculpa de la lejanía nada ha cambiado

de autoevaluación no ha habido un ejercicio de autocrítica si se prefiere sin un diagnóstico que lo avale el plan es solamente una huída hacia adelante tal vez se ha dado un intento de enfrentar esa readecuación muy cosmético e inmediatamente llevado al cajón de las buenas voluntades me refiero a una

que se titula compromiso social de la ertzaintza con la convivencia y los derechos humanos un

que hablaba de la formación en derechos humanos y bases éticas de una policía para la convivencia democrática que hablaba de la contribución que debía de hacer en este nuevo contexto socio político para consolidar una cultura de paz convivencia y respeto de los derechos humanos una iniciativa que establecía además un programa de actuación en cuatro acciones designación de un grupo de trabajo desarrollo de programa formativo sobre derechos humanos y bases éticas

nada de esto se ha llevado a la práctica ninguna de estas

se ha puesto siquiera en marcha una iniciativa esta doceava del plan de paz y convivencia

sin duda refiriéndose a este plan horizonte dos mil dieciséis una pretensión de coordinar uno y el otro que jamás se culminó por qué

reacia es esquiva a desarrollar esta iniciativa cuáles son las tensiones las reticencias internas o externas que prohíben que impiden que se materialice esta iniciativa del plan de paz el plan horizonte dos mil dieciséis

única y exclusivamente a cuestiones de personal de organización interna

para mantener idénticamente las mismas funciones una readecuación interna de la ertzaintza

un ejercicio de cosmética para que parezca que cambia algo cuando en realidad no está cambiando nada

galdu bat los sindicatos protestan y conjuran a este plan como origen de todos sus problemas puede que haya cuestiones de organización interna que les parezca inoportunos no lo pongo en duda tal vez sí que pongo en duda si les compete semejante atribución sin embargo tampoco están por un planteamiento de revisión en profundidad de los problemas que aquejan a la ertzaintza el problema

o escándalos menores se reduce tal vez a la imposición de nuevas condiciones laborales o más concretamente a condiciones saláriales con los cuales parece que los sindicatos están muy en contra un debate que la última vez que se plantearon en la era de ares en dos mil once

a golpe de talonario una situación a la que ahora

no puede acometer de la misma manera así se dibuja una pugna entre sindicatos que apelan al caos con la magnificación de hechos puntuales

enarbola estadísticas se debaten cuestiones accesorias pero ciertamente no se enfrenta el conflicto real que hay no se enfrenta el problema curioso además que explote ahora en un momento en el que ha desaparecido el que siempre se calificó

se evidencia entonces este problema pero se rehuye a dar un debate en profundidad se soslaya un debate intenso sobre qué modelo policial necesita este país sobre las ambiciosas reformas de raíz que se deben afrontar en la ertzaintza una tensión un conflicto entre una ertzaintza que requiere

utilizar una frase que suele utilizar un compañero suyo que no está el señor sémper que dice que estamos viviendo el día de la marmota y cuando le oía no sabía si estábamos en el veinticuatro de abril o estamos en el veintiocho de mayo

es una reproducción de lo mismo que se dijo en aquel momento en primer lugar quisiera

y continuando con una tradición de la ertzaintza de la que nos sentimos orgullosos el nuevo gobierno vasco asumió el reto de transformar la ertzaintza en una policía preventiva más cercana y a pie de calle tras el cese consolidado de la violencia terrorista de eta para

que finalmente se denominó horizonte dos mil dieciséis funtsezko hiru gauza bultzatzeko herritarren segurtasuna ikerketa eta informazioa eta kudeaketa

las líneas maestras de este plan fueron presentadas por la consejera de seguridad en la comisión de instituciones seguridad y justicia el día cuatro de febrero

de erandio para llevarlo a cabo se escogió una metodología participativa y tras definirse el equipo participante ocho ertzainas con cargos de responsabilidad es decir

interna se procedió al desarrollo de la reflexión estratégica

entre los agentes señalándose un plazo para recoger ideas de mejora sugerencias y o aportaciones plazo que se extendió por periodo de algo más de un mes y donde se recogieron un total de cuarenta y siete aportaciones desde veintisiete unidades distintas y de personas de todas las escalas y categorías incorporándose algunas

que posteriormente comenzó su implantación con distintas acciones y al ser un plan dinámico se sigue trabajando para actualizarlo racionalizarlo y adecuarlo a los nuevos tiempos fruto entre otras cosas de su implantación y de los cambios organizativos consecuencia del mismo

varias veces se ha hecho portavoz parlamentaria ha dicho que la organización de la ertzaintza ha empeorado que se ha reducido la eficacia policial

que no se les da herramientas para hacer la investigación que la prevención es un fracaso que han aumentado las quejas ciudadanas en definitiva todo está peor que reina la inseguridad el caos etcétera etcétera etcétera

que usted también utiliza para atacar al gobierno nosotros le vamos a dar datos algunos se lo facilitó la señora consejera el pasado veinticuatro de abril con motivo de su interpelación parlamentaria

en primer lugar según el último euskobarometro el sesenta y uno por ciento de los encuestados aprueban

lehenengoa baino hobea da eso es lo que dicen los ciudadanos y ciudadanas vascas tercer lugar la tasa de delitos y faltas continúa la tendencia a la baja y en el primer trimestre de este año dos mil quince ha descendido

y algo más del cuatro por ciento respecto a las faltas en relación a los datos del dos mil catorce en el mismo periodo consecuencia de ello en dos mil catorce se ha reducido la tasa de delitos y faltas por cada mil habitantes un dos coma diecisiete por ciento estando en una tasa de treinta y nueve coma sesenta y cinco delitos y faltas

de cuarenta y ocho en el estado español y muy por debajo de la media de los países más avanzados de la europa comunitaria cuarto lugar y en una materia quizás todavía más sensible en cuanto a la percepción social de la seguridad pública como es lo que la unión europea denomina delincuencia violenta

agresiones sexuales y robos con violencia o intimidación

con respecto al mismo periodo del año anterior teniendo en cuenta que en el ejercicio dos mil catorce ya se bajó más de un diecisiete por ciento seiscientos veintidós delitos menos quizás

fracaso tanto fracaso puede tener algo que ver en estos números las quejas ciudadanas

y deben ser importantes para corregir posibles errores y mejorar el servicio durante el dos mil catorce ascendieron a trescientos ochenta y ocho

pero no nos vamos a quedar con el dato porcentual sino con el dato cuantitativo estamos hablando que poco más de una queja por día

anterior poco más de noventa quejas de un total de más

en los cuarenta y uno centros de atención al público de la comunidad autónoma del país vasco azkenean ertzaintzak egindako inkestek

lortuz estos son los datos objetivos señora llanos sin entrar en otro tipo de valoraciones o apreciaciones

economía economicista ah otro dato significativo en ese periodo de alegaciones sugerencias aportaciones etcétera al que me refería al principio sabe usted cuántas aportaciones realizaron los sindicatos ninguna ninguna críticas en negativo todas pero aportaciones en positivo ninguna y el plan estratégico

y gran cantidad de acciones concretas para su desarrollo aportaciones en positivo para mejorar no simples descalificaciones de manera

y fácil es evidente es evidente y usted lo decía que hay mucho que mejorar pero con estos datos que le he expuesto realmente y sinceramente usted señora llanos cree que la ertzaintza es un caos y un desastre su eficacia es peor

por mucho que usted quiera presentar otro panorama con cautela y prudencia podemos afirmar que euskadi es un país razonablemente seguro y ello es fruto del trabajo esfuerzo y profesionalidad

el valor y el desarrollo de los planes estratégicos y de las personas responsables en cuanto a la organización de la estructura y a la organización del trabajo para el logro de estos resultados de ahí que nuestra enmienda inste al gobierno a que siga consolidando este modelo de gestión basado en la participación el liderazgo y la mejora continua y ajustados a las directrices y al plan general de seguridad pública de euskadi con el fin último de tratar de garantizar siempre la protección y la seguridad necesarias para incrementar el bienestar y fortalecer la convivencia

que es la misión que este plan establece a la ertzaintza como policía integral de euskadi tal y como recoge

una policía comprometida con la sociedad a la que sirve una policía para promover la convivencia la seguridad y el bienestar de las personas como también recogen los artículos tres y cuatro de la ley de policía vasca respecto

es evidente que eh bildu tiene muchos prejuicios

no voy a repetir hace pocas semanas con motivo de otro tema lo hacía cuál ha sido su actitud en los últimos años hacia la ertzaintza únicamente instarles

en esta materia en esta materia ir rápidos y a reconocer a la ertzaintza como la policía integral de este país dice que la ertzaintza tiene problemas que tiene una situación conflictiva una perversa inercia yo diría

por quién habla de que el problema es el modelo policial el nuestro está claro le acabo de decir cuál es la misión de la ertzaintza

cuál es el suyo a lo largo de estos últimos meses y con sus iniciativas

dice que se trata de una policía política no perdone cumplir y hacer cumplir las leyes persiguiendo a los que alteran el orden público y perturban la seguridad de los vascos y vascas

maneiro jauna zurea da hitza sí gracias presidenta únicamente para decir que con mi voto la moción original del grupo popular gracias eskerrik asko maneiro jauna

gracias presidenta buenos días de nuevo señorías bien para dejarlo claro desde el principio y para que no quepa ninguna duda los socialistas no venimos a esta cámara a ejercer de sindicalistas este parlamento no forma parte de ninguna mesa negociadora y desde luego ni los partidos ni los representantes políticos podemos usurpar

a los representantes legales de los trabajadores en este caso a los representantes sindicales de la ertzaintza pero vamos a apoyar la moción

es simple es muy clara y lo único que pide es que se atienda a esos representantes

muy importante de los trabajadores públicos y además señorías dentro de unos días dentro de pocos días vamos a tener de nuevo la oportunidad de escuchar de viva voz

no creemos de ninguna manera creemos que se puedan contestar por ejemplo

solo porque conservan sus puestos de trabajo y ganan además

de quienes dependen de empleadores privados alguna vez ya se lo hemos dicho desde esta le hemos dicho al gobierno que tienen ustedes un serio problema de gestión con esos empleos públicos con todos los empleos públicos y sobre todo

esos empleos públicos es porque hay un servicio público que prestar a la ciudadanía acabamos de verles un gesto con lanbide eso sí han iniciado ustedes una leve ciaboga con la convocatoria de la atendiendo al hasta ahora

posición unánime además de todos los sindicatos que ya les venían alertando desde hace tiempo que estaban incurriendo en un enorme pero no parece sin embargo que lo hayan hecho con otros empleados como por ejemplo los empleados de la radio pública y también con otros empleados como por ejemplo con los sindicatos sanitarios con los que mantienen y siguen manteniendo unos frentes abiertos sindicatos que mantienen por cierto otra postura también unánime

habla de privilegios no hablan de los recursos humanos de la organización necesaria para cubrir los servicios públicos que garantizan los derechos de los ciudadanos y no hablan tampoco de las condiciones en las que se prestan esos servicios

que creo que no cabe ninguna duda que el plan horizonte dos mil dieciséis tiene numerosas deficiencias tiene deficiencias de organización en el ámbito de la investigación en la gestión compartida de las comisarías o como prefieran si prefieren llamarle en los recortes que han derivado en la gestión compartida de las comisarías

tiene deficiencias en la atención directa a la ciudadanía tiene deficiencias en el tratamiento de las quejas pero eso

porque lo que de verdad interesa es que el plan horizonte dos mil dieciséis a los efectos de esta iniciativa de hoy es una propuesto organizativa del gobierno para un servicio público

que para que llegue a buen puerto debe contar con la colaboración y no con la oposición y desacuerdo unánime de los trabajadores afectados y debe también contar con un respaldo político suficiente que avale esa gestión y de momento no tiene ni una cosa ni la otra lo que sí tienen

es una propuesta permanente en la calle y muchas muchas y serias dudas no solventadas en esta cámara no sé si son susceptibles estas dudas de una enmienda de totalidad como decía la señora llanos pero sí tienen entidad suficiente

un replanteamiento del propio plan efectivamente señorías a este plan le queda un año en vigor pero en los más de dos años pasados desde que se aprobó apenas tenemos constancia más que de la retahíla de estadísticas de actividad policial que no se corresponden no se corresponden

ni con las vivencias diarias en las comisarías de los propios agentes que prestan los servicios ni siquiera con las propias

sus denuncias o cuales quiera cosas que tengan que hacer en estas comisarías y cuando los últimos datos indican que las quejas ciudadanas han aumentado en un sesenta por ciento en los últimos años algo habrá que hacer

hay muchos ciudadanos que han dejado de acudir a presentar quejas porque solamente para presentar la denuncia

bastante tiempo no vale no vale

esgrimir encuestas genéricas y hablar sobre la institución más valorada eso no tiene nada que ver hay que preocuparse sobre la eficiencia yo comparto con la consejera que nuestra policía debe adecuar sus tareas al afortunado escenario
en el que una banda terrorista y sus secuaces mesedez isiltasuna ser el centro

y creo también que el empleado público debe saber que su propia función

a necesidades de servicio a movilidad geográfica a movilidad funcional etcétera que debe ser adaptable perfectamente a cualquier circunstancia que exija

lo que a mí me diferencia de usted señora consejera es que creo que los empleados públicos lo saben perfectamente son perfectamente conscientes de eso y creo también al pie de calle tocando el suelo tienen las mejores antenas y si se me permite también los mejores radares para detectar aquello que no funciona pero eso

podrían entrarme dudas sobre esta cuestión como ha pasado en otros momentos de la historia de nuestra policía si los sindicatos mantuvieran posiciones diferentes

fundamentalmente porque se muestra una unidad de acción sindical que para sí quisieran muchos sectores de la actividad económica y productiva

aquellos que deben prestar el servicio de la seguridad a todos nosotros a todos los vascos a la ciudadanía vasca se está pidiendo que se haga caso

no se está pidiendo que se haga caso a todas sus exigencias no se está pidiendo que este parlamento se inmiscuya en la negociación en la que deben tomar parte el departamento y las centrales

cumpla su función protectora que garantice nuestra seguridad y que garantice el ejercicio de nuestros derechos y libertades y que lo haga contando con la aportación y la participación de los agentes ni más ni menos en diez días les vamos a escuchar

esa maniobra de acercamiento que tome el timón y aborde la ciaboga definitiva con interés señora consejera con interés para encauzar un conflicto que si no lo dejamos

y además ustedes saben que eso no es bueno porque el enquistamiento

el objetivo definitivo que no es otro que la prestación optima del servicio

gracias de nuevo y voy empezar con una serie de matizaciones

del plan dos mil dieciséis de que nosotros proponemos una enmienda a la totalidad no

como tampoco he hablado de que haya un caos sino que de algunos sindicatos aquí habían hablado de caos y por eso precisamente

que se elimine totalmente ese plan ni que se reformule sino que se introduzcan las modificaciones pertinentes y escuchando a todos los agentes posibles porque yo creo que aquí no sé si la confusión es intencionada o no intencionada pero los sindicatos hacen aportaciones

uno hacen reivindicaciones que vemos todos todas las semanas a las puertas de este parlamento sobre sus condiciones laborales

tan preocupado que es su grupo político con los derechos laborales de todos los funcionarios públicos y de los trabajadores por qué sin embargo

comprende perfectamente que los recortes y la situación económica difícil por la que estamos atravesando pueda hacer

para usted prima la condición de policía sobre la condición de trabajador y por eso pues bueno

la semana que viene es precisamente sobre eso sobre sus reivindicaciones laborales y yo aquí he expuesto las conclusiones

de su intervención en esta cámara relacionado con otro aspecto diferente que es la propia

que han venido a exponer sus quejas pero que no se las han podido hacer a la consejería

y pedimos la comparecencia en esta cámara para que todos los grupos políticos

fruto de noticias que vemos de agentes no sindicados que dicen que están viviendo el peor momento en cuanto a las condiciones de trabajo y de estructura y de organización

haciendo una recopilación de esta he puesto encima de esta mesa y claro que

le expuse a la consejera cuáles era a nuestro juicio las mayores

que funciona todo perfectamente que todo está fenomenal pero es que incluso usted en su iniciativa lo mismo

porque tiene muchas disfunciones tiene muchísimas disfunciones y yo

ocasiones de hablar después hoy aquí no he mencionado me he referido exclusivamente al plan horizonte dos mil dieciséis

yo cuando usted dice que la lejanía ya no hay la disculpa de la lejanía pero usted le llama disculpa

o en un puerto o en el puerto de herrera usted a eso tiene el valor de llamarle disculpa y es verdad que no era tan fácil patrullar por las calles porque existía esa amenaza

fruto de la enorme labor de este gobierno no la ertzaintza ha sido una institución muy valorada

y ha sido una policía cercana prácticamente desde su inicio y claro usted dice una nueva readecuación de la policía a qué

y no hacer nada las quejas es que solo han subido un treinta y uno por ciento un sesenta por ciento desde que se puso

si en otros sitios en los que ustedes forman parte de la oposición señores nacionalistas les dicen que esa institución ha aumentado la queja sobre la misma un treinta y uno por ciento estaban ustedes subiéndose por las paredes

no nefasta gestión vamos pidiendo la cabeza de cualquiera y aquí ha subido un treinta y uno por ciento a pesar de la dificultad que para tramitar esas quejas ya le digo tienen mire yo lo que propongo aquí es precisamente

y intentar que funcione mejor y hay cosas que de forma unánime más allá de las reclamaciones laborales que después tendremos ocasión

todos los sindicatos han puesto de manifiesto esas disfunciones y para mejorar lo primero que hay que hacer es

teniendo en cuenta la aportación de los sindicatos que son representantes de los agentes pero de los propios agentes también articulando fórmulas para escucharles también de la ciudadanía

hacer una reformulación de una estructura que en este momento está produciendo problemas y está produciendo disfunciones para conseguir garantizar lo que sí tiene que ser la función de la policía de nuestra policía que desde luego ha estado vinculada
eskerrik asko y comprometida con los derechos humanos desde hace muchísimo tiempo que es

politikoek bultzatutakoa una actitud que pudimos atestiguar hace una semana aquí en gasteiz contra una protesta pacífica desobediente ciertamente desobediente pero pacífica

en la toma de sus decisiones cómo opera como policía integral que ciertamente acepta todo tipo de encargos sin hacer

de cuál es la afectación que hace a los derechos humanos de la ciudadanía

este de euskal herria cómo afectan a la sociedad vasca cuáles han sido las decisiones que además se han adoptado en este parlamento y que afectan también a esos operativos

no duda en llevar a la práctica mañana hablaré de esto

pero sí que le quiero lanzar una pregunta a usted cuál es si es

para la convivencia de la cual habla el plan de actuación número doce del plan

esa iniciativa número doce que como le he dicho anteriormente no ha dado absolutamente ni un solo paso y que eso precisamente es lo que se verificaba el otro día en la actuación de la brigada móvil aquí mismo en gasteiz contra

queremos un servicio público de policía vasca cierto

actúe aquí de manera exclusiva con el repliegue de otras fuerzas de seguridad que no tienen hoy en día ningún papel en este pueblo

ver construido por las policías que hoy en día

de manera actual aquí en el nivel autonómico y también en el nivel local queremos

queremos enfrentar este conflicto pero lo queremos hacer en su totalidad y en su total profundidad

eskerrik asko señora llanos brevemente hace referencia a que los cambios deben hacerse desde el acuerdo y el consenso que hay que reconocer lo que no se está haciendo bien

hablaba del treinta y uno por ciento lógicamente treinta y uno por ciento no es lo mismo

números concretos sí quisiera que quedase claro que nosotros lógicamente nuestro planteamiento

sean trabajadores del tipo que sean policías o bomberos o lo que sea si bien hay actitudes que también tenemos que poner de manifiesto que no compartimos y que creo que no benefician precisamente

y la próxima semana lo pondremos de manifiesto también delante de los sindicatos que comparezcan realizar escraches a los representantes de la sociedad vasca a la que se supone tienen que proteger

trabajos creo que esas prácticas así como las críticas negativas e injustas sirven para ensuciar y desprestigiar una imagen

se ha conseguido que sea una de las instituciones más valoradas y de esto hasta ahora ya se han encargado

que hay mucho que mejorar y en esa línea se está trabajando y para esa línea se quiere contar con todos y con todas

no entre los efectivos y la consejería yo me ceñiría más entre los sindicatos y la consejería

ese conflicto laboral pues bueno aquí ha quedado de manifiesto la señora llanos dice que el plan horizonte dos mil dieciséis

de los recortes laborales y económicos planteados

de común acuerdo y asumiéndolo sino impuestas precisamente por el gobierno español de su mismo partido el partido popular señora llanos decía que es una policía política

le he dicho antes cuál es la misión de la policía hacer cumplir la ley y cumplirla y evitar que la seguridad pública sea alterada incumpliendo esa ley

garantizar ese estatus a pesar de que algunos han querido impedir ese desarrollo

lo que le decía usted ya que ha hecho alusión al debate de la semana pasada o hace dos semanas le decía que desde ahora bienvenido al club de ser defensor de los derechos humanos y nos parecía muy bien bildu se defiendan los derechos humanos pero lo que le decía es que hasta entonces dónde había estado dónde había estado y me salía con una pregunta una pregunta a continuación de eso con el tema del muro popular y yo le voy a responder también con otra pregunta muy fácil y muy sencilla

a lo que plantea respecto a la señora gallastegui habla de las encuestas genéricas lógicamente las encuestas genéricas

todos los casos son utilizables son utilizables y no solo cuando nos interesan en todos los casos hay que tenerlas en cuenta y también le debamos datos concretos

invade la ertzaintza no se corresponde con los datos
y la tasa de delitos que tenemos isiltasuna mesesdez respecto

y sabe muy bien de dónde proceden gran parte de las críticas sindicales que se han mencionado anteriormente quizás ha habido falta de transparencia

gracias de nuevo buenos días de nuevo señorías efectivamente señor zorrilla hay cosas que tampoco me gustan y que incluso puedo compartir con usted pero lo que sí es cierto

y ustedes como gobierno tienen la responsabilidad y la obligación de dar los pasos para intentar el acuerdo otra cosa es que luego el acuerdo no se consiga pero su obligación

como gobierno es intentar y si se puede conseguir que una institución como la ertzaintza no esté como está

nunca mejor dicho porque lo cierto es que día sí y día también se producen situaciones que dan muestra viva y elocuente de que el conflicto existe y no tiene muchos visos de momento de solucionarse

pero la del gobierno es la que es porque en definitiva es el empleador

laborales y económicos de los trabajadores por eso me ha sorprendido mucho que un miembro de la izquierda abertzale como usted señor arzuaga haya dicho sin rubor y sin rasgarse las vestiduras porque yo me he quedado atónita y dispersa pero absolutamente perpleja

que aquí hay cosas que se solucionan

que la negociación colectiva y la solución a una serie de discrepancias entre empleadores y trabajadores por cuestiones económicas se solucionan a golpe de talonario y eso está muy feo

a los trabajadores que se les compra y a los sindicatos

en los puertos americanos oiga un respeto por favor

y solamente he visto que los sindicatos reivindican lo que tienen que reivindicar y los empleadores están en la obligación de intentar llegar a acuerdos y si todos ponemos en posición

como lo más importante para poder llegar a acuerdos la negociación colectiva démosle vías porque lo que sí es cierto

jamás ni lo diré ni se me ocurre que eso también es otra cosa que hay que tener cuidado con las cosas que se nos ocurren decir

pero lo que sí digo es que hay un conflicto importante que tiene que solucionarse y que la principal la principal responsabilidad

es en el gobierno y que lo que le pedimos única y exclusivamente por lo menos desde el grupo socialista en esta iniciativa que ya hablaremos como digo del resto de asuntos concernientes a la organización

en otras iniciativas o comparecencias que tendremos ocasión de debatir incluso en fin lo que sea lo que le pedimos es que hable que hable y que intenten negociar por favor gracias

ya estamos eskerrik asko presidenta anderea egun on señorías y de manera muy breve
los socialistas presentamos esta iniciativa en este parlamento isiltasuna mesedez

a las numerosas peticiones que hemos recibido por parte de las personas con discapacidad visual grave residentes en nuestra comunidad autónoma al considerar estas que se encuentran en una situación de discriminación con respecto a personas con discapacidad visual grave residentes en otras comunidades

de esa tarjeta de aparcamiento de personas con discapacidad visual y pudiendo además usar esa tarjeta en nuestra comunidad autónoma no así a la viceversa

que vive en andalucía y tiene la tarjeta puede aparcar en el país vasco pero una persona que no ha conseguido esa tarjeta aquí ni siquiera puede aparcar tampoco en andalucía

para la promoción de accesibilidad del país vasco obliga a los poderes públicos a hacer una reserva de aparcamientos destinadas al uso exclusivo de vehículos de personas con movilidad reducida la recomendación del consejo de la unión europea de mil novecientos noventa y ocho

de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad con arreglo a un modelo comunitario uniforme de manera que dichas personas pudieran disfrutar

en todo el territorio comunitario de las facilidades que da derecho a la misma con arreglo a las normas nacionales vigentes

en materia del desarrollo normativo y planificación de los servicios sociales atribuidos por la ley cinco barra mil novecientos noventa y seis el gobierno vasco dictó el decreto doscientos cincuenta y seis barra dos mil que tiene por objeto la regulación de la tarjeta única de estacionamiento para las personas con discapacidad y su adaptación al modelo comunitario correspondiendo su concesión según lo dispuesto en el artículo seis a los ayuntamientos donde reside la persona interesada y de acuerdo con el procedimiento y modelo regulado en dicho decreto

tienen validez en todos los municipios de la comunidad autónoma vasca

y en los estados miembros de la unión europea en los términos que los respectivos ayuntamientos comunitarios tengan establecidos en materia de ordenación y circulación de vehículos el gobierno de españa aprobó en diciembre del año dos mil catorce real decreto que regula las condiciones básicas de emisión y uso de tarjeta de estacionamientos para personas con discapacidad el gobierno vasco

y no respeta la competencia exclusiva de euskadi en materia de asistencia social

interpuso un requerimiento al gobierno español para que derogue

del dos mil catorce el gobierno de españa respondió el trece de marzo rechazando dicho requerimiento amparándose en que la norma posee carácter transversal y que

facilitando el desplazamiento con automóvil de las personas con discapacidad y asegura

además dice que se trata de una regulación de los aspectos esenciales mínimos y que cada comunidad autónoma puede contemplarlos por eso nosotros hemos presentado esta iniciativa además quiero decir que en la actualidad

con discapacidad visual cuentan con un mínimo de siete puntos en el baremo de movilidad en araba y en bizkaia mientras que en gipuzkoa cuentan

seis dándose el caso de que en gipuzkoa una persona con seis puntos puede obtener una tarjeta de aparcamiento

esa también es una discriminación que existe en nuestra comunidad así mismo se da la circunstancia que la mayoría de las personas con discapacidad visual aguda aun teniendo un considerable problema de movilidad no llegan a los baremos de movilidad mínimos establecidos y por lo tanto

lo que les impide así mismo vuelvo a repetir aparcar en las zonas reservadas de otras comunidades autónomas sin embargo estamos viendo casos

en cataluña extremadura asturias etcétera sí están utilizando

motivos suficientes para que este parlamento inste al gobierno vasco a que sin la mayor dilación modifique el decreto

para las personas con discapacidad y se adapte al modelo comunitario uniforme

contemple específicamente a las personas con discapacidad visual grave como beneficiarios de las tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad hemos firmado un acuerdo con el grupo

y el resto de grupos ya nos han anunciado que van a apoyarlo por lo tanto consideramos que es una buena iniciativa

y ahora solo esperemos que el gobierno vasco a la mayor brevedad posible tenga

el gobierno está trabajando en la adecuación del decreto doscientos cincuenta y seis barra dos mil

por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad

establecer las condiciones básicas del régimen jurídico aplicable a la tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas con discapacidad con movilidad reducida a fin de garantizar la igualdad en todo el territorio del estado

en la utilización de la tarjeta de estacionamiento el real decreto contiene tres

las tarjetas de aparcamiento para las personas con discapacidad visual aguda además el mismo

y que presten servicios sociales de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia y por tercero introducción del supuesto de la tarjeta de estacionamiento provisional

es importante que las personas con discapacidad visual aguda tengan acceso a las tarjetas de estacionamiento pero evidentemente la adaptación implica tener en cuenta todas y cada una de las novedades a las que nos hemos referido y no se va a ceñir únicamente a la cuestión de las personas con discapacidad visual que por supuesto también

y que ya anunciamos tendrá forma de decreto en todo caso

sino que está previsto que también incorpore los requisitos y condiciones de uso así como los derechos y obligaciones de las personas titulares de la tarjeta de estacionamiento fijados en dicho real decreto pero además

concretamente el nuevo decreto pretende ampliar los supuestos de personas titulares del derecho

así en el contexto de las personas que presenten movilidad reducida está previsto que se incluya también a los menores de tres años que dependan de forma continuada de aparatos

o aparatos respiradores o que por su gravedad hayan sido valorados con discapacidad en clase cuatro o cinco por patología grave o muy grave

ahora sí perdón sí no intervengo brevemente desde el escaño

para mostrar nuestra posición favorable que desde el momento en que recibimos la iniciativa del grupo

tenemos claro está más que justificada y con la intervención de la señora sarasua está claro que

cuanto menos mejor porque se está produciendo un agravio comparativo a las personas afectadas y que están pendientes de lo que hagamos hoy

el grupo enmendante haya llegado a un acuerdo con el proponente y sin más lo vamos a apoyar gracias